muchas gracias señora presidenta como todos ustedes saben nosotros llegamos a un acuerdo

con el gobierno vasco un acuerdo que sirve para aprobar los presupuestos del gobierno para este año dos mil diecisiete

desde la responsabilidad que entendemos que cuando las cosas empiezan a ir un poco bien o un poco mejor de la situación mala en la que estábamos desde las administraciones lo que no hay que hacer es entorpecer ni poner piedras en el camino sino todo lo contrario favorecer lo más posible

y esa creación de empleo hay que dar confianza a las empresas y hay que asegurar la financiación necesaria de los recursos

algunos les gustaría que fuera más y que incluso algunos grupos han dicho que claro se incrementaba poco el presupuesto respecto al ejercicio anterior pero nosotros tenemos que decir que si no se aprobara este presupuesto hoy pues contaríamos con ciento cincuenta millónes de euros menos que el ejercicio pasado para gastar porque es evidentemente que se autorizan ciento cincuenta millónes de euros más

pasado nosotros llegamos a este acuerdo primero

nosotros tenemos un modelo y es evidente que otros tienen otros modelos y el gobierno tiene uno un poco

en decidirse por dónde quería llegar a acuerdos o con quién quería llegar a acuerdos y evidentemente más allá

en la comisión de hacienda correspondiente nuestro acuerdo es el que firmamos con el señor consejero en el que se recogen las prioridades políticas que va más allá evidentemente de las partidas presupuestarias y de las enmiendas que nosotros presentábamos

tampoco llegamos a un acuerdo pleno con el gobierno vasco porque ya dijimos desde el principio que este no era nuestro presupuesto hay muchas partidas en este presupuesto con las que no estamos de acuerdo nosotros entendemos que hay mucho gasto corriente

especialmente en determinados organismos y sociedades públicas pero también manifestamos nuestra voluntad de acuerdo y también sabemos que cuando alguien quiere pactar o está dispuesto a pactar pues sabe cuáles son los límites que tiene cada uno es muy fácil decir nosotros queremos llegar a un acuerdo pero si pongo condiciones

que ya sé que no me las van a poder aceptar pues cada uno luego puede explicar y vender

pero en este caso nosotros desde el minuto uno dijimos y pusimos de manifiesto nuestra disposición a llegar al acuerdo con unos presupuestos que algunos tachaban que si la cuantía de las enmiendas era poca o mucha unos presupuestos que son de más de once mil millónes de euros unos presupuestos en el que más del cincuenta por ciento

de esos once mil millónes de euros se dedica a pagar sueldos unos presupuestos en el que la partida

la segunda es el gasto de farmacia cerca de ochocientos millónes de euros la tercera es la rgi que con el complemento

jarraitu mesedez muchas gracias señora presidenta no me parecía que eran beneficiarios de la rgi pero en cualquier caso reitero

quinientos millónes de euros prácticamente el cinco por ciento del presupuesto

que encender la luz o levantar la persiana de todo el resto de la administración

de estos presupuestos y como decía había dos modelos uno que se planteaba desde algunos partidos hay algunos partidos que consideran

que son muy progresistas porque si gastamos más

y digo gastamos más en gasto social

eso es muy bueno y nos va muy bien nosotros pensamos todo lo contrario ya lo dije el otro día y es evidente que nosotros no estábamos de acuerdo y por eso digo que otro de los motivos de llegar al pacto que era evidentemente muy susceptible de empeorar el presupuesto que nos había traído el gobierno vasco si se llega a acordar con otros grupos que por ejemplo planteaban y plantean y siguen planteando hoy incrementar

en un quince por ciento no es cierto que se recorta en este presupuesto se incrementa un uno

que por cierto se incrementa bastante más que muchos sueldos y muchas pensiones

que nosotros la aceptamos aunque tenemos que decir que tampoco nos parecía correcta tal y como venía y digo que

con perdón de algunos grupos se incrementa y desde luego nosotros lo hemos incrementado sustancialmente lo hemos incrementado

de euros nos interesa y mucho la conciliación de la vida familiar y laboral y evidentemente

y sobre todo nos interesa el empleo la creación de empleo que entendíamos que en este presupuesto se podían incrementar esas partidas para el plan de industrialización el apoyo a los emprendedores

reflejan un incremento de más de dieciséis millónes de euros en este presupuesto para esas materias concretas y como decía incrementamos también

tanto en educación en sanidad en cultura o en cooperación al desarrollo que también nos parece muy importante y es una partida que este grupo ha defendido

hemos defendido siempre sin olvidarnos de las víctimas del terrorismo y como decía hay partidos y hay grupos que planteaban otras cosas hay grupos que planteaban como he dicho

que no la hace sostenible hay grupos que plantean

que no llegue el ave nosotros estamos a favor bueno hay grupos progresistas en este parlamento

en esta comunidad yo conozco pocos si estuviéramos hoy en el siglo diecinueve algún grupo en esta cámara se opondría al tren de vapor por los mismo argumentos que se están dando

por poner un ejemplo pero bueno como estamos en el siglo veintiuno y nosotros sí estamos a favor del progreso del país

y que mejoren la calidad de vida de todos los ciudadanos pues evidentemente nuestro modelo era muy distinto a ese que estaban planteando otros grupos y por último

desde la simple recaudación se equivocan no voy a repetir el debate que llevamos ya varios días con este tema se equivocan lo vimos el otro día

se equivocan al pensar que los impuestos sirven solo para recaudar los impuestos tienen la finalidad de recaudar pero tienen la finalidad de recaudar no asfixiando la economía y a la gente sino todo lo contrario

porque muchas veces bajando los impuestos se recauda más y subiendo los impuestos a veces se recauda cero y como ejemplos llevamos puestos ya unos cuantos

a reiterar en lo mismo es importante que los vascos tengamos presupuestos

a los gastos de la administración de las administraciones pero es más importante todavía que eso sea sostenible

si no es sostenible es cuando de verdad vienen los recortes aquí cuando algunos hablan de recortes y del partido de los recortes lo que habrá que explicarles

hay algunos que salvamos el estado de bienestar social que otros con sus propuestas parece que lo que quieren es cargárselo porque no hay dinero para pagarlo incluso cuando algunos nos dicen hay que revisar las deudas que tenemos a ver si son justas o no luego lo que están planteando es que nos endeudemos más y que por lo visto nos preste dinero

y como van a ser tan generosos luego nos van a seguir prestando dinero bueno las cosas no funcionan así en sus casas no funcionan así y desde luego en la administración no funciona así y es por este motivo que nosotros hemos llegado al acuerdo nosotros nos vamos a abstener en la tramitación de estos presupuestos vamos a permitir que tenga presupuestos esta comunidad autónoma mejoran sustancialmente

pero sobre todo nosotros entendemos que la dirección

pues hace ya un mes es el correcto y es el que debería de seguir

evidentemente vamos a votar en contra como ya hicimos en la comisión de hacienda de todas las enmiendas que presentan tanto bildu como podemos y eso permitirá evidentemente que los vascos tengamos presupuestos

y que si seguimos esta senda yo entiendo que incluso los ingresos fiscales

no haría falta hacer reformas fiscales que impliquen subir impuestos a los ciudadanos sino todo lo contrario a lo mejor hay que hacer planteamientos de vamos a ver qué impuestos se rebajan

a las arcas públicas y entre todos nos salga más barato pero tengamos más dinero para financiar más proyectos muchas gracias eskerrik asko damborenea jauna

para dar luz verde al instrumento económico que asegura el impulso de las políticas públicas en nuestra comunidad

la solidaridad y la cohesión social que muestra el compromiso y la responsabilidad de este gobierno bipartito con la sociedad y con sus prioridades

para la recuperación económica para la creación de empleo para el mantenimiento de las políticas públicas en sanidad en educación y la protección social un presupuesto que por mucho que les pese consolida derechos sociales

con la misma sensación con la que empezamos su tramitación hace mes y medio y es que ningún partido tenía un proyecto alternativo y que probablemente

hoy saldríamos con un mínimo rechazo y un amplio acuerdo en la incorporación de diferentes propuestas porque quienes llegan hasta este día con algunas enmiendas reservadas

que no deben de ser tantas porque se han perdido por el camino de esta tramitación setecientos dos enmiendas hoy tan solo discutirán o defenderán en este presupuesto

entre los dos grupos que no han querido alcanzar hoy un acuerdo han respaldado el setenta y cinco por ciento de las mejoras que ha propuesto el partido popular a las cuentas presentadas han avalado el setenta y cinco por ciento de las propuestas

eso solo puede ser incoherencia o postureo si ustedes fueran coherentes para que esas noventa y ocho enmiendas que han sido avaladas por unanimidad

o bien de elkarrekin podemos o su abstención puedan ser incorporadas en coherencia estos grupos deberían al menos no votar en contra tal vez todavía esta mañana nos depare alguna sorpresa inesperada y que esa sorpresa sea que quienes respaldan mejoras presupuestarias no se oponen

de momento este trámite esta vez nos ha dejado esa curiosidad debe ser

que algunos décimos que se ha abierto en euskadi donde hay que perder el miedo a pactar se está empezando a instalar porque esto no ocurría antes recordarles que en la pasada legislatura eh bildu jamás respaldó

aunque fuera para financiar acuerdos alcanzados con ellos eh bildu se opuso

se opuso a la enmienda de que se utilizara un solo euro en fracking y también se opuso

e innovación hemos tenido alguna sorpresa más en esta tramitación por ejemplo que los modelos alternativos de sociedad que dicen defender tanto

en el departamento de seguridad y para otros en la reducción de sueldos de altos cargos porque a eso iban el grueso de sus enmiendas porque la parte voluminosa en la cuantía que no en el número es la que se refería al tren de alta velocidad

pero que ellos saben ambos grupos saben que es solo para dar apariencia para maquillar los importes totales que dicen movilizar

no pueden contar y no somos nosotros quienes lo décimos ni quienes lo repetimos sino los servicios de esta cámara que han dejado por escrito en los informes a la tramitación presupuestaria que esas propuestas son enmiendas de carácter político de efecto presupuestario porque al ser una encomienda de gestión que se compensa por el cupo no son partidas que puedan ir a financiar ningún otro gasto ni que se

otra parte llamativa en la que también coincidían ambos grupos era la de eliminar de forma directa las partidas que financiaban organismos públicos por ejemplo eliminaban cualquier gasto en el ente vasco de la energía cualquiera incluido el salario de sus trabajadores pero no promovían ni promueven ninguna iniciativa legal que elimine dicho organismos así que que también parecen tan lustrosas esas que algunos han justificado con un razonamiento tan profundo como araban putzurik ez todo lo que cabe en una pancarta pero no en una enmienda pues tampoco son aportaciones válidas es más bien postureo luego sí hay unas enmiendas coincidentes en ambos referidas a la renta de garantía de ingresos y donde les reconozco que tienen ustedes un argumento algo más sólido aunque llama la atención que entre ambos difieran en cuánto supone de subir las cuantías en un ocho por ciento

pero aparte de esa duda en cuanto a las cuantías le reconozco que eso sí es una diferencia nosotros ya hemos explicado las razones por las que hemos optado

como se hace en navarra con el apoyo por cierto de ambos grupos y estableciendo un mínimo superior también al que está establecido en navarra

no cuentan con otro tipo de derechos sociales que sí tenemos en esta comunidad autónoma como es el derecho a la vivienda nosotros se lo hemos explicado ustedes

pero ni siquiera en esto diremos que hay una alternativa y no la hay no la hay porque eh bildu no lo situó como línea roja cuando comenzó este trámite al margen de su discurso de fondo que se lo reconozco hasta el momento de registrar estas enmiendas

e inexcusable para intentar incorporarse al acuerdo presupuestario fue después cuando necesitaron vestir su enmienda a la totalidad cuando recuperaron ese argumento pero bueno esto son cuestiones que pasan cuando uno necesita justificar sus posturas

también estaba justificada ustedes la justificaban en que no hay suficiente inversión en investigación y desarrollo a pesar de que el presupuesto recogía de saque

y nos sorprendimos con ese planteamiento y ver unas enmiendas parciales que plantean ustedes para reducir las cuantías para proyectos de innovación e investigación en el sector primario donde contamos con empresas públicas como azti

que han sido un importante apoyo para mejorar la actividad pesquera

y hoy no las van a defender ya en este pleno porque además y ustedes lo saben el presupuesto que se aprobará hoy aun a pesar de sus votos mejorará

la inversión en innovación y desarrollo prevista hay más cuestiones que ustedes han reconsiderado de esas doscientos noventa y cuatro enmiendas presentadas iniciales

y que por cierto representaban una cuarta parte de las mismas y son las que se referían al departamento de seguridad único departamento por cierto que ya reducía sus gastos de salida debe ser que ahí es donde está su modelo alternativo

les daba igual que fuera la partida para los pantalones de los agentes que el mantenimiento de los helicópteros o incluso el sueldo de los funcionarios dependientes del departamento fueran estos ertzainas o no

hacia la policía vasca porque el único argumento que ustedes utilizaban para estas reducciones clonado

era que seguía los parámetros del proyecto de presupuestos del dos mil trece un proyecto que no fue más que eso proyecto porque nunca se aprobó porque toda la oposición coincidimos en rechazarlo hasta que hicimos otra cosa mejor

en aquella fecha en este asunto otra cuestión significativa y que también se ha dicho es la actitud que tienen ante cualquier infraestructura el modelo alternativo

cueste lo que cueste y eso es lo que hacen con el tav aunque como ya le he dicho esta propuesta suya no afecta a las cuentas en sí

será que les hemos convencido con las explicaciones en el trámite parlamentario y me estoy refiriendo a la enmienda en la que pretendía la supresión de la partida para el metro de donostialdea y todo porque ese grupo

ciudad está en contra curiosamente esta no pero proponían una alternativa otra iniciativa que también se les ha caído por el trámite se les ha caído mucho

esta enmienda que ustedes proponían y me estoy refiriendo a la que ustedes nos hacían para el brt o bus exprés en san sebastián

están ustedes de acuerdo de hacerlo en vitoria verdad porque aquí en este ayuntamiento se ha diseñado la movilidad en la ciudad y la apoyan aunque para ser coherentes ustedes deberían como mínimo no votar en contra de la partida que va a hacer posible en estos presupuestos

ido realizando hay una que también nos llama mucho la atención y es la de aumentar el gasto en los programas de empleo juvenil lo cual creo yo

supone reconocer explícitamente que existen esos programas aunque hace un par de semanas en el pleno se empecinaron en negarlo y por ello propusieron la necesidad de una ley de juventud la misma a la que ustedes se opusieron hace siete años para lo que además proponían

llega a este pleno todo esto la verdad yo creo que tiene bastante de postureo de intentar justificar que son los que se preocupan por determinadas cuestiones pero que al final realizan propuestas que no responden a otro modelo sino que curiosamente como este es el caso avalan el planteado por el gobierno en fin

paso ahora a las propuestas de elkarrekin podemos y me voy a centrar primero en la parte de los ingresos intentaron ustedes hacer malabares para calcular a ojo

una propuesta de trazo gordo improvisada de última hora injusta sin cobertura legal regresiva y basada en la urgencia exclusiva de justificar la necesidad de presentar una enmienda a la totalidad

ante cualquier acuerdo algo que quedo en absoluta evidencia en el pleno pasado el jueves donde desestimamos su ocurrencia porque eso es lo que era una

no el día que llegaron a este parlamento sino cuando el gobierno presentó a esta cámara una propuesta con ingresos y gastos que casaban esa es la única verdad que está detrás de esa propuesta en su estreno ustedes han perdido una ocasión para demostrar que efectivamente pueden tener

que fue lo que hicimos los socialistas en la pasada legislatura antes que cualquier otra cosa proponer un debate monográfico sobre los ingresos sobre la fiscalidad y otro sobre los gastos sobre el empleo no tuvimos suerte a que se nos atendiera es verdad pero al final en el dos mil trece

pudimos recalcular los ingresos y pudimos mejorar los gastos y este año en dos mil diecisiete

que sean necesarias con serenidad sin urgencias desde planteamientos

en cuanto a los gastos que nos proponían en sus enmiendas no les voy a repetir los argumentos referidos al tav ni a las sociedades públicas

ustedes habían presentado cuatrocientos sesenta y siete enmiendas la gran mayoría eran enmiendas de bulto tan de bulto que el propio grupo proponente solo va a defender hoy en este pleno catorce enmiendas abandonan en el camino cuatrocientos cincuenta y tres

porque la gran mayoría de ellas se centraban en determinadas cuestiones por un lado los sueldos de altos cargos por otro lado los gastos en locomoción de los distintos departamentos no les importaba

para comprobar si se estaba respetando el cumplimiento de las condiciones laborales también se centraban en el interés que tienen por reducir el gasto en que se compre prensa y publicaciones hasta tal punto llega la obsesión en esta partida

que a la estructura de turismo y comercio les dejaban ustedes trescientos once euros para todo un año en fin

en que los departamentos organicen cursos en general aunque estos sirva para enriquecer sus tareas para mejorar sus conocimientos y para avanzar en la mejora de los servicios públicos

si le suman ustedes a esto el ataque indiscriminado a las partidas de comunicación y publicidad aunque esas mismas se destinaran a una campaña de concienciación sobre el tráfico o a la promoción del turismo pues la verdad

quedaba del modelo alternativo de las enmiendas que ustedes presentaron un modelo que debe de basarse por ejemplo

esas que luego generan empleo se debe realizar solo desde la iniciativa privada que lo público no está para eso y se lo digo por si no se acuerda porque también lo han dejado en el camino presentaron una enmienda

la sociedad pública que se dedica a gestionar suelos industriales para la compra de terrenos y solares para eso según su modelo cero euros hay que destinar cero euros

no estamos de que no nos equivocamos en lo que le décimos es fiel reflejo las catorce

que refleja el modelo de presupuestos de podemos para euskadi por un importe escaso de catorce millónes de euros su modelo se reduce según lo que llega a este pleno a poner setecientos mil más en cultura ciento noventa y seis mil euros más en educación

tres millónes en vivienda cuatro coma ocho en sanidad y cinco millónes para la fuente de espalación la verdad para este viaje no hacía falta tanta alforja

sinceramente los socialistas creemos que en una revisión de sus planteamientos desde bases más sólidas

un mayor margen para los acuerdos y de hecho no descartamos esa posibilidad de que en futuras cuentas ustedes puedan hacer aportaciones desde los píes en el suelo

porque no fue su programa electoral el que consiguió la confianza suficiente para gobernar pero sí la fuerza suficiente para influir y eso influir requiere un esfuerzo para encontrar puntos en común

al que sí le han votado el setenta y cinco por ciento de las enmiendas que han presentado

presenta el equipo que gobierna que parece que no quieren votarle ni una sola salvo que hoy tengamos alguna sorpresa y en las votaciones tengamos alguna rectificación de postura estaremos expectantes el grupo socialista no apoyará lógicamente las enmiendas presentadas por elkarrekin podemos ni eh bildu lo fuimos justificando una a una en las diferentes comisiones que se produjeron

argumentos y de sus modelos y por tanto aprobaremos el proyecto de presupuestos presentado con las incorporaciones realizadas con el acuerdo presupuestario con el partido popular muchas gracias

para dos mil diecisiete y vemos que nada ha cambiado es más las complicidades y la fraternidad entre la entente neoliberal cada vez están más fuertes

de las autonómicas y la realidad no hace sino darnos la razón aún recuerdo cuando en campaña el señor aitor esteban señalaba

que un acuerdo con el partido popular era imposible hoy el mayor de los temores de la ciudadanía vasca se hace realidad

y el partido socialista aprobaran los presupuestos de la mano del partido más antisocial de esta cámara y de todo el estado español hoy el parlamento vasco

gracias al regalo del partido popular que para no permitir unos presupuestos más sociales más justos vende barato su voto al peor postor lo hemos dicho ya varias veces este flirteo no tiene ni el principio ni el final en estos presupuestos de euskadi

primavera de mil novecientos noventa y seis en la que el señor anasagasti y el señor mayor oreja llegaron a un acuerdo para que el partido nacionalista vasco facilitara

obras faraónicas como el tren de alta velocidad tampoco debemos engañarnos

olvidar que el cambio de cromos sigue a la vuelta de la esquina en la próxima derivada que serán los presupuestos generales del estado

y el inviable el partido nacionalista vasco y el partido popular siempre han sabido remar conjuntamente en favor de las elites económicas y por qué no seguir remando

a través de la ley de presupuestos se determina la política que un gobierno llevará a cabo en un año natural y en el caso de la comunidad autónoma de euskadi esta ley de presupuestos de dos mil diecisiete determina también la política que el gobierno vasco se plantea llevar a cabo durante la legislatura número once

durante la misma así la piedra angular que determinará las acciones a ejecutar por el gobierno vasco parte de un diagnostico muy muy alejado de la realidad siendo este un proyecto de presupuestos inadecuado e innecesario a la hora de ofrecer soluciones reales a los problemas de la ciudadanía vasca una ley de presupuestos con la que nosotros y nosotras

el gobierno vasco lleva cerca de dos meses con la consigna de que son unos presupuestos sin holguras debido a la coyuntura económica pero que aun así crecen un uno coma dos por ciento respecto a los del año anterior y como bien dice un dicho popular de la lengua castellana quien hace la ley

por eso hay que explicarle bien a la ciudadanía que los presupuestos de dos mil diecisiete no crecen por una mayor justicia social donde los más pudientes este año vayan a pagar más no

de euskadi para dos mil diecisiete es simplemente por un mayor poder de endeudamiento que aprobaron mariano rajoy

así el endeudamiento bruto de euskadi para dos mil diecisiete crece en ciento cuarenta coma seis millónes de euros un incremento del once coma cuatro por ciento respecto a dos mil dieciséis

intactos personalmente opinamos desde nuestro grupo parlamentario que es intolerable que en una comunidad autónoma donde la previsión del crecimiento

para dos mil diecisiete se sitúa en el dos coma cinco por ciento y en la que existe capacidad de generar y de administrar recursos propios el espacio para el gasto solo se haya aumentado un uno coma dos por ciento gracias a una mayor capacidad de endeudamiento e hipotecando así el futuro de la sociedad y en general de la juventud vasca nos hemos encontrado en medio de un proceso de negociación en el cual nada servía porque todo estaba vendido

y el partido popular para la perpetuación de sus nada diferentes modelos económicos se estaba allanando desde el comienzo de la legislatura y pese a las negociaciones e incluso algún fuego cruzado bastante cómico

el objetivo de esta legislatura ha quedado claro que el partido nacionalista vasco pueda gobernar tranquilo y sin contar con la parte izquierda del arco parlamentario durante cuatro años a cambio de perpetuar la estabilidad de la derecha española en madrid durante otros cuatro años condenar no solo a euskadi

de más austeridad y de modelos de empleo precarios aliarse con aquel partido al que el partido nacionalista vasco prácticamente

el enemigo del desarrollo para euskadi recordemos al señor erkoreka hablando del pie en pared

a las élites a costa de las capas más desfavorecidas de la sociedad y para poder continuar mercadeando con las competencias y leyes que nos corresponden

todo esto con el apoyo de un partido socialista que gracias a su aportación ínfima al presupuesto

aún más que los partidos con proyectos neoliberales acuerden en apenas dos semanas los presupuestos de todo un año para los cuales nuestro voto obviamente es negativo el conjunto de enmiendas parciales que presentamos

trataban de seguir las líneas principales de nuestras propuestas para unos contenidos diferentes a aquellos presentados en el proyecto de ley de presupuestos

un proyecto de ley de presupuestos de corte continuista y que refleja a la perfección las políticas neoliberales llevadas a cabo en los últimos años por el partido nacionalista vasco un proyecto de ley de presupuestos en el que no se puede apreciar ningún avance en materias sociales en relación a la riqueza generada en el territorio

las bases de las enmiendas parciales que desde elkarrekin podemos hemos presentado lógicamente ninguna ha sido aceptada se sustentan en las siguientes líneas en los siguientes ejes básicos para un presupuesto

es una orientación del gasto por criterios de utilidad social esto es la eliminación o la reducción de aquel gasto innecesario superfluo o con un

con personas asesoras con gastos de protocolo publicidad y relaciones públicas

y gastos de estancia o gastos informáticos hablaban ustedes antes del tav bueno las partidas que nosotros hemos eliminado

son las partidas de sobrecostes no justificados y los tramos aún sin iniciar

una auditoría del impacto social y económico del proyecto y lo hemos utilizado no para gasto social por ejemplo sino en un ejercicio de realismo lo hemos utilizado para la mejora de la red ferroviaria convencional vasca

nuestros ejes es la reducción del uso de gasto externalizado y derivación de provisión de servicios públicos a entidades externas a la administración general o

es sabido que el incremento de intermediarios reduce la eficiencia incrementa el gasto y la explotación de los trabajadores y de las trabajadoras el gasto

abre la puerta a lógicas de clientelismo y no a lógicas de gestión eficiente de la provisión de los servicios públicos el proyecto de ley de presupuestos pone

que más allá de la propaganda el gobierno vasco no apuesta seriamente por los y las trabajadoras del sector público vasco el gobierno vasco ha destruido

una desmesurada precariedad entre los y las trabajadoras de la administración de euskadi donde hoy en día uno de cada tres está en situación de interinidad por ejemplo

el treinta y cuatro coma ocho por ciento en educación el treinta y ocho por ciento alta temporalidad como instrumento de privatización con una administración paralela de más de cincuenta y cinco mil trabajadores y trabajadoras que desde elkarrekin podemos

sin embargo no entendemos cómo sin hacer una apuesta por el empleo público de calidad el número de altos cargos aumenta en diecisiete miembros

en un doce coma dos por ciento y la plantilla de asesores también aumenta en un veintiocho por ciento

considerábamos necesario reducir en parte las partidas económicas destinadas a gastos informáticos concretamente aquellos gastos que hemos podido determinar que están destinados al abono de licencias de software privativo

que la administración pública vasca ha de hacer un esfuerzo por invertir en economía local en economía de este país y eso pasa en nuestra opinión por invertir en desarrollo la economía local

en euskadi eliminábamos así aquellas cuantías al respecto del software privativo que tienen herramientas equivalentes

aumentábamos también la inversión en la oficina de software libre

que debe ser el servicio que dé mantenimiento a estas herramientas y también apostábamos

destinados a aplicaciones ad hoc para la administración

del desarrollo lo obtengan pequeñas y medianas empresas locales

y no a grandes multinacionales y consultorías que además de desarrollar software privativo

por la baja calidad de sus condiciones laborales el tercer eje consistía en reforzar los instrumentos y recursos para la protección

y de la ciudadanía que en peor situación se encuentra estamos asistiendo a una apuesta

y de capacidad para ejercerlos y desde elkarrekin podemos entendemos que unos buenos presupuestos son aquellos que protegen y ponen en el centro

dejan de lado a las clases más vulnerables cronificando así la pobreza de cada vez más personas situándolas al margen de la sociedad y tratándolas como meros porcentajes para uso

consiste en reforzar la intervención desde la perspectiva de género en todo el presupuesto y la lucha contra las violencias machistas

para elkarrekin podemos es insuficiente el presupuesto que el gobierno vasco dedica para las políticas de igualdad opinamos que hay una gran incoherencia

y los recursos que se destinan y todos sabemos que la voluntad se acompaña de recursos porque solo con la intención no se generan hechos concretos

nos gustaría que todos los departamentos y organismos autónomos tuvieran más recursos específicos para la igualdad y también nos gustaría terminar

el gobierno tiene diez organismos autónomos y emakunde es el antepenúltimo en el ranking del gasto previsto para dos mil diecisiete los once millónes

son algo menos del cero coma uno por ciento respecto al total de la cuantía presentada por el gobierno en este proyecto de ley de presupuestos

que nos hace dudar muy seriamente de la prioridad que dicen ustedes que tienen hacia las políticas de igualdad el quinto eje sería reforzar nuestros servicios públicos cuando hablamos de educación

es que a veces nos preguntamos qué entiende el gobierno por educación de calidad nos hubiese gustado que ese escaso incremento en educación se hubiese visto reflejado en reforzar la red pública

que el departamento de educación sigue sosteniendo dos redes educativas por igual la pública y la privada los presupuestos siguen reflejando

no es la apuesta del gobierno no es su prioridad la escuela pública vasca carece de proyecto y desde elkarrekin podemos tenemos claro que la educación pública

que el derecho a la educación sea una realidad asegurando la cohesión social la educación vasca necesita más recursos más recursos destinados prioritariamente a gastos de centros

en medios desfavorecidos a satisfacer demandas de la red pública y ampliar la oferta pública de cero

pero recordemos que no solo es importante cuánto se invierte sino y en cómo se invierte por eso desde elkarrekin podemos

con dinero público educación pública en definitiva la educación es un servicio público cuyo garante último debe de ser el estado

por parte de los poderes públicos garantizar una educación de calidad y compensadora de las desigualdades para toda la ciudadanía vasca por tanto es necesario reforzar la escuela pública y garantizar que todas las redes asumen los mismos compromisos por igual apostamos por una regeneración educativa que conecte con nuestra manera de entender la política y la sociedad una educación equitativa

e innovadora una educación pública vasca de calidad integral laica

y otro modelo de distribución de los recursos de acuerdo a las necesidades reales de la gente de nuestra tierra no entendemos por ejemplo la asignación de ciento veinticuatro millónes

a servicios realizados por otras empresas exteriores son externalizaciones privatizaciones asignación

tareas asistenciales o de pruebas complementarias de diagnóstico o consultorías externas no estamos de acuerdo

preparados para desarrollar sino todas la mayoría de las actividades asignadas a empresas externas no estamos de acuerdo con asignar

de todos y de todas nosotras no estamos de acuerdo con el supuesto éxito de la colaboración público privada creemos que al revés la experiencia internacional demuestra que en dicha supuesta colaboración el que pierde siempre es el sector público en nuestro modelo de gestión

y debe situarse en el centro de las estrategias de promoción de salud otro modelo de gestión otro modelo de distribución de recursos

menos vertical otro modelo de prioridades un modelo más comunitario y más eficaz los municipios las redes sociales de salud las redes locales de salud las organizaciones sociales y su alianza con el sistema de salud

y bienestar de la ciudadanía son demasiadas las presiones que tienen los sistemas de salud por parte de las multinacionales de farmacia

para no fortalecer los criterios independientes del trabajo clínico y de las acciones de salud desde el sector público

nos encontramos ante un modelo de gestión cultural que solo atiende a una visión de la ciudadanía como consumidora pasiva de servicios y productos culturales sin embargo

debe hacer lo necesario para que la participación sea el eje de la misma empezando desde los propios presupuestos y ahí es donde se centran nuestras enmiendas parciales

metimos en el proyecto de ley de presupuestos en materia de cultura y euskera ya que las presentadas por el gobierno a nuestro entender son del todo insuficientes injustas e incapaces de dar respuesta a las demandas del sector y de toda la ciudadanía vasca el séptimo eje sería

la mejora de las condiciones y la calidad del mismo así como en orientar ese gasto e inversión en la consolidación de una política económica

el modelo de desarrollo económico y por último cabe decir también que los presupuestos están hipotecados por la necesidad de acometer

para finalizar desde elkarrekin podemos hemos realizado tres enmiendas al articulado que van en coherencia con la valoración y el discurso que venimos haciendo sobre los presupuestos hay que invertir en las personas la primera enmienda

y es urgente revertir los recortes sociales que nunca han estado justificados en el año dos mil once se tomó la medida de bajar un siete por ciento

que se ha venido consolidando año a año desde entonces y que se tomó como una medida excepcional

en el argumento de la crisis la crisis según sus propios datos de previsión de crecimiento se ha superado y este dos mil diecisiete contamos con una previsión

por lo tanto no vemos justificación posible para mantener

para cuadrar los datos limitado planteamos mediante revertir ahora un cuatro coma cinco por ciento del siete por ciento recortado en el año dos mil once

casi el tres por ciento restante la segunda enmienda

es porque entendemos que mientras no finalice el proceso de reforma consensuado de la renta de garantía de ingresos no es procedente ni justo ni ético emprender una reforma de la normativa el artículo veinte de la ley de garantía de ingresos

claramente que la referencia para el cálculo de la prestación es el salario mínimo interprofesional y por lo tanto no vemos que proceda

se acordó el pasado quince de diciembre buscar los consensos necesarios para emprender esta reforma de forma pausada y compartida con agentes institucionales sociales y sindicales y la tercera a la disposición adicional octava es porque entendemos que tal y como hemos defendido la primera de las enmiendas que no tiene sentido mantener un recorte

un recorte injusto la disposición adicional octava planteaba una modificación de ley que era más amplia

vigente porque protegía más en un tiempo en el que el precio medio de la vivienda en euskadi es de más de setecientos euros es necesario posibilitar

a las unidades de convivencia generalmente familias de más de dos miembros así proponemos volver a la regulación original que establecía

a percibir de prestación complementaria de vivienda para unidades de convivencia de dos o más miembros no es a pesar de lo que se dice para tergiversar

o que tenga la base en las ayudas económicas y no lo es más que nada por dos simples cuestiones la primera

no es una ayuda es un derecho y por lo tanto hay que defenderlo como tal porque no hemos venido a hacer política para permitir que se desmonten los derechos mientras observamos en silencio y la segunda es que los derechos como

unos mínimos que permitan su inclusión social pasa por apostar por la igualdad por la justicia y por la cohesión social

coherentes con dicha apuesta desde nuestra perspectiva la calidad en el empleo es un imprescindible pero independientemente de eso

y que apueste por los derechos para garantizar una vida digna a todas las personas que residen en euskadi en general el resultado que

es el siguiente ni un presupuesto más social

presupuesto más racional ni un presupuesto más equitativo ni un presupuesto más sensible a las demandas de la ciudadanía

sin superar los límites de gasto y sin necesidad de endeudar al gobierno vasco y sobre todo señoras y señores escuchando a la ciudadanía y poniendo sus necesidades en el centro de nuestros quehaceres y repito una vez más la frase de aitor esteban en septiembre de dos mil dieciséis cuando decía que un acuerdo con el partido popular es imposible de aquí como decía javier krahe

ser de toda confianza incluso muy convincente lo que antes ser muy mal

y hoy resultar excelente hombre blanco hablar con lengua de serpiente eskerrik asko eskerrik asko bollain jauna

breve dentro de estos cinco minutos que nos quedan a nuestro grupo no me voy a referir ni a las enmiendas ni a partidas concretas de mayor o menor cuantía me gustaría hablar de lo que en realidad se va a aprobar finalmente que son

que han acordado los tres partidos que se sientan a la derecha de la cámara entre otras cosas porque cualquiera de las enmiendas que hubiesemos presentado desde nuestro grupo sabíamos que iban a ser rechazadas por ese acuerdo que había

exigía exclusividad y por lo tanto nuestro grupo no pretende con más o menos enmiendas cuales serían los presupuestos que haríamos si nosotros gobernásemos por ejemplo lo que sí sabemos es que los presupuestos que van a salir son producto del acuerdo de estos tres partidos

son un modelo que identifican no solo al gobierno sino a los tres partidos que lo respaldan tres partidos que se autodefinen

ideológicamente cuando hablan de ellos mismos pero que sorprendentemente han llegado a un acuerdo rápido muy rápido sobre una cuestión que es fundamental

que deberían al menos suscitar un mayor debate entre quienes supuestamente piensan diferente miren yo vengo

en el ámbito de la negociación colectiva en el ámbito sindical donde lo que pretendemos es llegar a acuerdos no solo con quien piensa diferente sino

contrario y buscan en esa negociación objetivos contrarios

y sabemos que cuando se pretende negociar con quien piensa diferente se puede llegar a buen puerto si no se despachan las cosas en dos días en dos días es imposible

hace dos semanas a nosotros el señor azpiazu nos despachó en dos días en dos reuniones de manera muy educada lo vuelvo a decir pero en dos reuniones y por eso nosotros insistimos en que no había voluntad de intentar negociar con nuestro grupo parlamentario

éramos exigentes y poníamos una serie de cuestiones encima de la mesa cuestiones que como todo el mundo sabe cuando se va a negociar luego se mueven en la

pero sabíamos y se corrobora que era mucho más fácil el acuerdo con el partido popular por dos cuestiones que vuelvo a repetir una porque

en casi todas las votaciones y otra porque había pues un cruce de necesidades el partido popular no tiene la mayoría suficiente en el congreso de los diputados para aprobar los presupuestos del estado

para conformar gobierno y ahora del partido popular para sacar adelante estos presupuestos nosotros insistíamos en hablar de fiscalidad

porque seguimos pensando que la fiscalidad de este país un país que tiene competencias en fiscalidad sigue consistiendo en que fundamentalmente los impuestos los pagamos las

y las medidas que nosotros proponíamos en cuanto a fiscalidad a ustedes les parecen que no eran de recibo porque dicen que nos acogimos a una

pero resulta que nuestra fórmula excepcional no sirve para debatir sobre los presupuestos pero sí en cambio podemos tener unos presupuestos con disposiciones adicionales

no seré el más sabido en estas cuestiones pero una disposición adicional segunda que lleva unos recortes que eran pensados también para un momento excepcional y llevamos ya unos cuantos años con ellos esa es la contradicción de estos presupuestos que no se atreven con los que más tienen con los que más ganan pero en cambio sí se atreven con los que más lo necesitan unos presupuestos que mantienen que van a mantener un sector público

porque son unos presupuestos que siguen el patrón que se impone desde las instituciones supra estatales a los países del sur de europa consistentes en una carga impositiva fundamentada en los trabajadores

impositiva sobre las empresas y las rentas de capital una contención del gasto y una disminución de los sectores públicos en favor de sectores privados que además cada vez precarizan más la vida de las y los trabajadores es decir se marca

para la acumulación del capital sobre la explotación

término ya simplemente quería aprovechar la ocasión en vísperas del catorce de abril para recordar a las mujeres y hombres

hoy volveremos a escuchar que estos presupuestos son los más sociales

hace escasa semana escuchamos lo mismo de los que presentó el gobierno de rajoy será casualidad

muy hábilmente eliminan ustedes los más de setecientos ochenta y ocho millónes de euros de amortización de deuda

para maquillar sí el peso del gasto social en estos presupuestos porque gasto social

sino a partidas concretas gasto social es recuperar las condiciones laborales del personal docente en educación gasto social es invertir en que en los hospitales haya más personal o simplemente luchar para que las residencias tengan capacidad para mantener en condiciones dignas a nuestros mayores en definitiva para que un presupuesto sea realmente social se trata de que se atiendan de verdad las necesidades de la sociedad

este presupuesto no lo hace no lo hace porque mantiene en vigor los recortes en derechos sociales que desde la legislatura de lópez están en vigor

los incrementa por la puerta de atrás no solo porque mantienen el recorte sino porque profundizan en él a través de la no aplicación

al salario mínimo interprofesional desde su implantación y actualmente unida estrechamente a la huelga de hambre que mantienen en la plaza de las mujeres en bilbao personas sí en esta situación no lo hace porque nuestra universidad va a tener que hacer encaje de bolillos una vez más con un presupuesto que no reconoce su papel en el presente y en el futuro

para atender a todo el mundo como se merece ante la falta de personal no lo hace

en barracones y porque los y las profesoras seguirán teniendo que suplir a sus compañeros más allá de lo razonable porque no hay sustitutos no lo hace

con un lanbide que no acaba de arrancar y una maraña de entes que nadie sabe a ciencia cierta a qué se dedican y así

pero en definitiva lo que está claro es que estos presupuestos una vez más siguen la senda del inmovilismo la resignación y la espera a tiempos mejores y no es que lo diga yo es que las palabras del propio consejero azpiazu en su primera comparecencia en la comisión de hacienda y presupuestos nos daban lugar a dudas tras el revés recaudatorio decía

y que como consecuencia de la propia senda de reducción del déficit el margen existente para dos mil dieciocho y dos mil diecinueve será también particularmente ajustado

y tristeza inacción porque ante ese revés recaudatorio

por parte del propio consejero a favor de una reforma fiscal

de los medios suficientes para desarrollar las políticas públicas que este país necesita han vuelto a optar por esperar por esperar a los resultados de una reforma fiscal que pactaron oh sorpresa los que hoy respaldan este presupuesto una reforma fiscal que nos ha traído hoy hasta ahí a unos presupuestos con apenas trescientos mil euros de lo que esperaban de la recaudación en el dos mil dieciséis teniendo en cuenta ese revés recaudatorio esperan obtener casi trescientos sesenta y nueve millónes de euros más de lo que realmente aportaron las diputaciones para el sostenimiento de las políticas comunes en el dos mil dieciséis la verdad es que tras tres años de incumplimientos resulta difícil creer que este año se cumplirá

parece muy claro que también tendremos medias verdades en torno a la aplicación del gasto

ekin beharko diogula pero este gobierno

que es prioritario aumentar la recaudación porque la evolución actual de los ingresos no permite sostener las políticas de gasto de las administraciones que ha llegado el momento para un aumento de la presión fiscal palabras del consejero ha elegido como compañero de viaje al partido popular que aunque se parapete

no subir impuestos a las clases bajas y medias ya sabemos qué hace cuando las circunstancias le permiten desarrollar su modelo de política fiscal

que lo correcto sería decir neoliberales lo que ustedes hacen cuando pueden desarrollar su modelo de política fiscal es beneficiar a los que más tienen y ocultar tras frases como el dinero tiene que estar en los bolsillos de la gente recortes en sanidad

y recortes en las políticas sociales porque claro cuando ustedes hacen eso no hay dinero para todo solo hay dinero para los de siempre y solo hay dinero para lo de siempre porque ese es su modelo ese es su verdadero fin reducir al máximo el sector público y beneficiar a los empresarios amigos y si esto es lo que ustedes quieren partido nacionalista vasco y partido socialista

porque en euskal herria bildu en cambio creemos en un sector público fuerte que garantice

hurrengo urteetan berriz ere estu eta larri ibiliko zara otro año más perdido otro año más perdido con unos presupuestos conformistas y en esta ocasión acordados con el partido líder en recortes líder en austeridad

de los derechos sociales la frase de no hay para muchas alegrías con estos compañeros de viaje le puede durar unos cuantos años más señor azpiazu pero lo más triste es que mientras ustedes no hacen nada o lo que es aún peor se limitan a cumplir el expediente

esta sí que realmente no da para muchas alegrías

un veinte por ciento de la población está en riesgo de pobreza o de exclusión social un quince por ciento más de lo que había en el año dos mil ocho

que viven con menos de quinientos cuarenta y uno euros al mes y hay ochenta mil personas cuyos ingresos no superan los trescientos treinta y dos euros

es curioso que estemos en índices de producto interior bruto similares a los del ejercicio dos mil ocho

es más desde el inicio de la crisis se han perdido el diez por ciento de los empleos

díganselo no hay para más díganles no hay para más díganles vuelva usted mañana

con todos sus miembros en paro a los miles de jóvenes que siguen en el paro

con pensiones inferiores al salario mínimo interprofesional datu makroekonomikoak

eraikitzeko desde euskal herria bildu hemos presentado a este presupuesto doscientos noventa y cuatro enmiendas parciales por un total de seiscientos siete millónes de euros enmiendas orientadas a la ordenación del gasto en tres ejes básicos el eje económico es decir

el eje del fortalecimiento de los servicios públicos y por supuesto una apuesta clara

enmiendas realistas enmiendas realizables y enmiendas responsables enmiendas para corregir en cierta medida las carencias de este presupuesto

ni sus prioridades son las nuestras pero sí creíamos posible subsanar en parte esas carencias y poner estos presupuestos mirando también al futuro

los efectos perniciosos de las políticas económicas del partido popular enmiendas hechas desde la responsabilidad desde el realismo y desde el rigor

pero no ha podido ser porque su tristeza señor consejero embriaga todas las cuentas porque no se trata solo de dar una respuesta a estos problemas a los problemas de hoy se trata de poner las bases para el futuro en definitiva se trata de construir un país más justo gure zatikako zuzenketa guztiak baztertu dira

izan da y no ha podido ser porque el gobierno ha optado por el partido popular por un acuerdo aparentemente barato

veintinueve millónes del dinero que no tenía ningún fin concreto van a conseguir sacar adelante unos presupuestos sin cambios y así se nos trasladó el pp

porque eso es lo que tenemos hoy aquí encima de la mesa unos presupuestos donde los equilibrios entre el partido nacionalista y el partido socialista no se han visto alterados estos son los presupuestos del tripartito a la madrileña unos presupuestos

y los sabañones son para la ciudadanía vasca que está ahí en la calle unos presupuestos donde el café para todos se convierte en un cortado aguado

y sin tener en cuenta para nada las necesidades de las clases populares vascas los presupuestos de un gobierno que quiere trasladarnos su tristeza

pero que antes paga favores sin desmayos sí señorías en estos presupuestos volvemos a ver partidas para fundaciones afines para asociaciones del entorno de los partidos firmantes o para financiar obras ordinarias de competencia municipal en pueblos donde gobiernan o

sin ningún rigor por el simple hecho de contentar al partido con el que se acuerdan los presupuestos hay dinero para coros

regionales y una vez más se nos dice que no hay dinero para todos que no da más que la caja pero en cambio sí lo hay para cuestiones que no son competencia de este gobierno hoy partido nacionalista vasco partido socialista y partido popular van a sacar adelante el presupuesto de dos mil diecisiete un presupuesto sin ambiciones porque este gobierno ha renunciado activamente

los recursos necesarios para desarrollar políticas públicas que realmente necesita la sociedad vasca unos presupuestos para el salir del paso

y acuciados por las necesidades políticas de un gobierno en minoría unos presupuestos que lamentablemente nos acercan más a las políticas del estado español y del

auténticas paganas de su política de tristeza económica

cuando son presupuestos apoyados por los dos partidos que han gobernado en madrid alternativamente dos partidos que han llevado al estado a la extenuación y a las políticas sociales

salgan de su tristeza salgan de su tristeza económica y traten de entender que va siendo hora de que miren de una vez hacia este país y que no miren hacia fuera mal que les pese al partido popular o al partido socialista los problemas de murcia

y gipuzkoa o a lo mejor sí y es por eso que han firmado ustedes un acuerdo señor azpiazu desde euskal herria bildu queremos demostrarle que se pueden acordar políticas para la distribución de la riqueza

desde las cuestiones presupuestarias para ello estaremos aquí otra vez a finales de año porque nos tocará otra vez a finales de año señor azpiazu diciéndole que si sale

estaremos dispuestas a volver a extenderles la mano

en el periodo dos mil catorce dos mil dieciséis se rompe el riesgo de consolidación de la dinámica

en la centralidad y que hace posible realmente un acuerdo entre opciones ideológicas y partidos distintos un presupuesto además que tiene unas prioridades absolutamente claras que es mantener consolidar y mejorar

el modelo vasco de protección social y como prioridad máxima de la legislatura luchar contra el desempleo lograr más empleo y para ello adoptar medidas que propicien la reactivación económica de euskadi luego

podremos analizar datos de fiscalidad en relación a lo que usted estaba diciendo que aquí quienes más trabajan son los trabajadores recordaba usted que procedía del ámbito sindical

que tengo cuarenta y siete años llevo en política desde los cuarenta y he sido durante más años delegada sindical elegida por mis compañeras y mis compañeros que político no sé de dónde ustedes

todos al igual que ustedes procedemos de esa sociedad civil de ese pueblo que luego nos ha elegido y paso ahora

de espaldas a la realidad social

nuestro grupo parlamentario logró un escaño más su grupo parlamentario logró tres escaños menos escuchen pues al pueblo y sean ustedes los que no actúan de espaldas a la sociedad

los ejes de vuestro proyecto eta zuzenketak

dos partida del departamento ocho salud

otros servicios un millón de euros más partida veintitrés mil seiscientos nueve de la sección seis hacienda y economía

amaieran europar batasunak ateratako índice de competitividad regional ustedes conocen

europea que presentó la comisión europea a finales de febrero

que se extraen o las conclusiones que podemos extraer

la competitividad de doscientos sesenta y tres regiones europeas

nosotros estamos en el puesto ciento diecinueve a nivel global pero estamos en la duodécima posición con mejores puntuaciones en sanidad y educación y si estamos en la

una es por el déficit de las infraestructuras y todo eso que les estoy diciendo yo lo tienen ustedes en el informe de competitividad que lo pueden leer por el déficit de infraestructuras

sistema sanitario y por nuestro modelo educativo porque precisamente esos son los que están tirando hacia arriba en la posición y

porque otras regiones han desarrollado sus infraestructuras en ese sentido

en la cuestión de la nueva red ferroviaria vasca en los trenes de alta velocidad probablemente cuando nosotros terminemos

nuestro nivel de competitividad en relación con las infraestructuras y la posición global será mejor pero no hagan el discurso en relación con el ámbito sanitario y educativo en ese sentido porque no somos nosotros son indicadores

que realmente creemos que es una posición a destacar en el ámbito europeo

y ustedes buscaron persuadir a eh bildu para rechazar las cuentas vascas eta bere erantzuna

creyó a partir del acuerdo de presupuestos en álava que podía convencer a eh bildu

eta berak erantzun eban y cuando vimos eso nos movimos

islas balearesen dos mil trescientos ochenta y dos guztietan

modelo socioeconómico alternativo está lleno de contradicciones lleno de contradicciones y es absolutamente complicado para ustedes llevarlo al ámbito de la concreción ustedes tienen que mantener posiciones maximalistas

en su cabeza y en su discurso como antes se lo han recordado existe esa diferencia tan grande de modelo socioeconómico

en relación con el ámbito público privado y eso que ustedes dicen que no se debe recurrir a las externalizaciones

sanidad desde el ámbito de la salud pública en algunos hospitales se están haciendo están llenos de contradicciones yo he sido concejala en un ayuntamiento gestionado o gobernado por bildu

externa donde las carreteras se limpiaban se quitaba la nieve y se hacían obras menores con una empresa externa

se hacía con servicios exteriores y una empresa externa y ustedes están haciendo la vida imposible e impidiendo que muchas políticas públicas de este gobierno se desarrollen por ahí eso es hipocresía

esa diferencia tan grande en la fiscalidad que ustedes decían del cambio de modelo pues yo tengo aquí los dos acuerdos que el partido nacionalista vasco

en esta materia en el ámbito de en las juntas general de álava con ustedes el gobierno del partido nacionalista vasco y partido socialista de euskadi y el que hemos acordado también el gobierno vasco del partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi

bueno no tenía que haber dicho para que adivinaran ustedes a ver cuál es de quién y si notaban diferencias pero bueno

y políticas sociales no podrán suponer disminución de la recaudación no podrán suponer desarmonización del sistema tributario

la fiscalidad debe tener dos objetivos complementarios por un lado obtener los recursos fiscales necesarios para financiar gastos e inversiones del gobierno vasco

especialmente para la juventud vasca lo mismo y dice cualquier planteamiento de reforma fiscal deberá contemplar un amplio acuerdo que no traslade a las rentas medias y bajas una merma de sus ingresos

lo mismo aquí solo que también a bajas eskerrik asko eskuzabaltasunagatik

que los más sociales y más sensibles con las clases más desfavorecidas somos nosotros pero bueno

se nos ha calificado de antisociales

somos los de los recortes los líderes en recortes y cuando menos me sorprende porque se lo han dicho antes

con el voto o la abstención favorable de uno de los dos grupos por lo tanto el setenta y cinco por ciento de nuestras enmiendas eran lo suficientemente buenas o lo suficientemente sociales o no estaban a favor de las élites económicas

para que prácticamente nos aprueben las enmiendas que habíamos pactado con el gobierno vasco señor bollain

a desmontar derechos permítame dudarlo

porque otros que ya estamos o estábamos esos derechos que usted defiende tanto los creamos sí sí usted me disculpara pero nosotros los creamos sí incluso cuando no se llamaba renta de garantía de ingresos sino salario de inserción bastante antes sí sí lo creamos los que estamos porque le voy a decir ustedes no estaban

que no votaba y tampoco lo votaron que yo sí me acuerdo y esa ley que ustedes defienden tanto hoy en día

recordé yo el otro día también pero lo votamos el partido socialista y nosotros entonces no se sí han venido a desmontar derechos

desmontar económicamente si se hacen planteamientos económicos insostenibles para la ciudadanía

y eso es lo que ocurre con los planteamientos que ustedes nos han hecho yo voy a sacarle un poco la cara al señor consejero si no les importa

hemos hecho un pacto en dos reuniones además lo hicieron en madrid

no nos hemos reunido nada verdad y además ha sido muy barato el pacto y tal

llamadas no sé cuántas y correos electrónicos varios porque también les puedo decir que estamos en la era de las tecnologías

se pueden intercambiar documentos entre más de dos personas y lo del barato

las enmiendas que ustedes han mantenido digo por decirlo así con independencia del texto que nosotros planteamos en su día

porque son los que más dinero gastan y mariano rajoy dice lo mismo

pues se supone hasta ahora yo cuando les oía a ustedes

se medía en función del dinero que se gastaba entonces estos presupuestos son los que más dinero gastan hasta la fecha

son los que más gastan y los del gobierno de españa también son los que más gastan yo siento que les moleste pero esa es la realidad

o mal si se gestionan bien o mal porque claro cuando ustedes nos dicen

en el tercer mundo en vías de desarrollo los chavales a clase en barracones bueno y la sanidad es un desastre la educación es manifiestamente mejorable tenemos un problema de que faltan maestros o faltan niños porque igual esa es la pregunta que nos teníamos que hacer o que nos teníamos que empezar aquí faltan de verdad maestros o faltan niños

claro es mejorable es mejorable

con ese mantra que nos dan somos los que más gastamos en educación tenemos la mejor educación

somos los que más gastamos y no tenemos la mejor educación es mejorable sí

y me habla de los problemas de murcia yo no sé qué problemas tienen los murcianos

pero no se ha metido con él y por eso nosotros repetimos hace mucho tiempo y voy a repetir un discurso que nosotros venimos haciendo hace mucho tiempo usted lo ha dicho hemos perdido noventa mil empleos

de los buenos y a lo mejor algunas centrales sindicales

es igual porque no es el tema y ese es el problema que tenemos claro la creación de empleo estable y de calidad del bueno

desde hace muchos años y el otro día yo estaba dando aquí los datos a treinta y uno de diciembre del año pasado se han ido más empresas del país vasco a madrid que las que han venido aquí facturan mucho más que lo que ha habido tres comunidades autónomas que perdieron empresas

una éramos nosotros otro era navarra desde que gobiernan ustedes y la otra es cataluña

comunidades autónomas de españa que han perdido empresas y empleos del bueno

y que hay que atraer la inversión y cuando nosotros décimos

empleos de calidad estables y se han creado muchos cuando nosotros vemos que los jóvenes vascos esos que todo el mundo dice que son los más preparados de la historia que evidentemente lo son si quieren buscar un empleo

tienen que salir fuera de aquí porque aquí no se crean puestos de trabajo para ellos esa es la prioridad que nosotros planteamos pero hace muchos años que lo estamos diciendo y el problema que tenemos luego es el de la natalidad por eso le decía hacen más maestros

igual empiezan a sobrar maestros si seguimos a este ritmo

pero sería una mala noticia por ejemplo ese ahorro y por lo tanto como esa es la prioridad que nosotros tenemos

a las familias y la creación de empleo ahora también les digo una cosa

atraer empresas y empleo en sitios inestables políticamente o presupuestariamente inestables

que en las comunidades donde el nacionalismo es muy importante pues no sea precisamente un foco de atracción para las empresas

nos decía el portavoz de elkarrekin podemos que nada ha cambiado hombre algo sí de cuatrocientos noventa y cinco enmiendas nos han quedado catorce algo ha cambiado algo nos hablaba de una hermandad

el setenta y cinco por ciento de las propuestas realizadas por el partido popular para aprobar los presupuestos del gobierno vasco han sido respaldadas o por ustedes o por eh bildu algo no cuadra en esa necesidad que tienen ustedes de armar el discurso con lo que han hecho en la comisión de economía y hacienda cuando se fueron realizando

ostras revisen el diario de sesiones revisen las votaciones que votaron a favor de ello les pareció que era una buena idea y apoyaron es una de las enmiendas que no salió rechazada ahora voy a tener que revisar no sé si estaban ustedes cansados y no controlaban ya sus votaciones

un debate presupuestario con catorce enmiendas tan solo reservadas y al final pues hay que hacer frases de quinientos que es un poco lo que se ha dedicado el portavoz de elkarrekin podemos o igual

y nos da para más gasto porque desde luego del detalle de su intervención no lo vamos a conseguir hablaba luego de aportación ínfima

gestos porque usted debería de mirarse al espejo cuando sale de casa me ha traído usted aquí catorce enmiendas en este pleno

más que estas catorce enmiendas que usted ha decidido que son las que modifican y solventan los problemas de los ciudadanos de euskadi estas no otras

dónde se han quedado los ejes de podemos desde luego en este pleno no

el empaque suficiente para poder defender todo aquello que habían hecho a bulto al principio pues también puede ser pero lo que han traído esto

en esto que es lo único que se debate y se vota hoy en este pleno

que el dinero del tav y no se lo digo yo léase los informes que acompañan al presupuesto no lo pueden utilizar ustedes para ninguna otra cosa para ninguna

está bien yo sé que necesitan sumar para decir que han hecho ustedes una movilización importante pero saben que no es cierto no se engañen ni engañen que no es necesario verdad me ha gustado una cosa de usted y es que ha hablado en pasado dice apostábamos

lo que ha pasado que apostaban desde el trámite en que esto empezó hasta el que hoy hemos terminado porque

salía un segundo portavoz a explicar alguna cuestión y decía yo no vengo a hablar aquí de las catorce enmiendas que se han traído a este pleno

lo reconozco pero la verdad es que yo sí que creo que es necesario

en este pleno para que votemos para modificar el programa de gobierno haber escuchado a la ciudadanía y solucionar sus problemas y es que aquí se aprobase

que pondríamos ciento noventa y seis mil euros en educación solventado el tema de educación

lo que usted ha venido aquí a decir tres millónes en vivienda cuatro coma ocho en sanidad y cinco millónes

con esto con estas enmiendas su modelo está incorporado al proyecto de presupuestos del gobierno vasco eso

las cuestiones que han hecho catorce enmiendas no hay nada más

sociales y ciertamente creemos que lo son que se atienden las necesidades de los ciudadanos se han ampliado las partidas de gasto social y usted sabe que es así

que se podrían ampliar más igual pero se han ampliado se han ampliado y eso es algo que ustedes no pueden negar me hace gracia cuando dicen que utilizamos datos para maquillar cifras pues ya se lo he contado yo antes que usted saldría a hablar en esta de que ustedes precisamente utilizan el tav y las sociedades públicas para maquillar lo que es su modelo

si no atacan a lo que es el tav y a las sociedades públicas y resulta incoherente resulta incoherente que me hable usted del empleo público me hable de la calidad en el empleo público se lo ha recordado la portavoz del pnv pero creo que es necesario que usted sepa que ustedes aquí retrasar ofertas públicas de empleo en el departamento de educación vamos de lo de seguridad me ha parecido que venían hasta tarde después de las enmiendas que han prestado el veinticinco por ciento destinado a sanidad que no hace falta ni que compremos pantalones pues si no hacen falta pantalones no harán falta agentes por tanto esa mira no me parece ni tan incoherente

retrasar una oferta pública de empleo bueno eso es un poco lo que tiene cuando hay que armar discurso verdad discurso pero debajo de ese discurso no hay tanto me hablan ustedes de la reforma fiscal el gran tema tema que por cierto seguiremos hablando fuera del debate presupuestario sin las urgencias de rellenar el cómo justificamos aquí nuestra postura etcétera una reforma fiscal que en este momento ha permitido que haya once mil cincuenta y nueve millónes bueno

digo yo que de esos cálculos de esos tres años usted sabe que algo les toca

aceptaban aprobaban unos cálculos

fin esto de tirar la piedra y esconder la mano es algo que hemos venido escuchando los que hemos estado en diputaciones forales en los últimos años pero hombre asuman que dentro de ese conjugar cifras también estaban ustedes y no se ponga nerviosa por el tema de poner en marcha una reforma fiscal ni justifique la postura de hoy en lo que pudiera pasar mañana aunque no sabe ni lo que es

en fin lo fácil va a ser cuando nosotros aquí podamos debatir fuera de lo que es este ámbito presupuestario

el tema de los ingresos y esté tranquila porque lo va a hacer porque el convencimiento que tenemos el partido nacionalista y el partido socialista de lo que significa la política fiscal

hará que este parlamento pueda discutir y pueda debatir de lo que van a ser las próximas medidas

a las diputaciones forales a los territorios

lo único que le digo es que usted me ha dicho y ya con esto creo que voy a ir terminando y concluyendo que hacían ustedes propuestas realistas realizables y responsables

unas doscientos enmiendas pues no serían ni tan realistas ni tan realizables ni tan responsables porque tampoco las defienden en este pleno y a este pleno llega lo que llega un trocito un poquito más largo de las de podemos pero no se crea usted que mucho más lo suyo es solo esto

no hay nada más estos son los presupuestos de la comunidad autónoma con todas sus partidas todas sus partidas que usted dice

para bastante café pero usted prefiere quedarse en su discurso en ese discurso del no de no llegar al acuerdo de que no se puedan incrementar determinadas partidas

de todas estas partidas presupuestarias dicen que van a tener tiempo que tendremos tiempo de reflexionar mire

y no desde luego para salir de la tristeza que no necesitan salir de la tristeza sino de la comodidad en la que se encuentran del no por el no tienen una oportunidad de hacerlo

es decir no hay que quedarse en la trinchera anímese den un salto y salgan fuera que fuera les digo yo que no hace tanto frío eskerrik asko

iba a empezar con la señora castelo pero como me ha dicho que va a venir ahora mismo

decía usted que esos derechos haciendo referencia al ingreso mínimo de inserción lo crearon ustedes los aquí presentes yo creo que no es verdad lo que usted dice y que esos derechos se crearon

y se mejoraron gracias a una huelga general y a una ilp pero creo que no deben ustedes desoír

aunque como vemos así lo hacen y se ponen una medalla que no les pertenece

con su conciencia sabíamos que vendrían a cuestionar y a intentar

apenas nos escucharon hemos cometido algún fallo señora gorospe sí seguro que sí pero

nos hablan de responsabilidad y de poco realismo pero no me gustaría dejar pasar la oportunidad de preguntarles por qué

destinada al programa gaia de la asociación bizitza berria nosotros

pero acaso entra dentro de su buena gestión

a una entidad social que hacía una labor imprescindible pero que a día de hoy

decía usted también en el pleno de treinta de marzo cito textualmente por cierto señor martínez

ha dicho que los comedores transporte limpieza bajan sí bajan porque las licitaciones han sido menores no porque el servicio sea menor

la cuestión no es pagar más por pagar más sino que la gestión sea buena el partido nacionalista vasco tiene claro qué es una buena gestión

que va a provocar que incrementen el grado de esfuerzo trabajadores y trabajadoras por lo tanto que va a incrementar su grado de explotación y sobre todo el de las trabajadoras el de las mujeres

de sectores ampliamente feminizados sabemos

que ustedes van a tener que cargar con ello decía usted también señora gorospe en el pleno del treinta de marzo le ofrecía al gobierno vasco para llegar a un pacto veinticinco millónes de euros muchas de las propuestas que ustedes estaban planteando

las podían haber abonado con ese importe las podían haber abonado muchísimas ya dijimos nosotros y nosotras desde un primer momento que seríamos exigentes

está claro que nosotros y nosotras no somos el partido popular y también que nosotros y nosotras no entendemos el debate político y el debate de contenido de los presupuestos como una simple subasta de pescado

que para el partido nacionalista vasco el límite se encuentra en veinticinco millónes de euros y el primer partido que más se acerca a esta cifra y acepte la oferta es el que le apoya el gobierno vasco ha aceptado modificaciones presupuestarias del partido popular por valor de veintinueve millónes de euros lo que representa

de la cuantía total de los presupuestos para nosotros y nosotras como décimos

del presupuesto no puede ser una subasta donde si me das veintinueve millónes de euros para gastar en mis cosas me abstengo y doy el visto bueno a un presupuesto se lo recuerdo que en lo que ha invertido el partido popular también está entre otras cosas conceder sesenta mil euros a la fundación popular de estudios vascos

ayudas para sus únicos tres feudos en euskadi como pueden ser uno coma tres millónes a laguardia cero coma noventa y cinco millónes

de ebro no me gusta mirar a españa pero usted ha hablado de valencia de

y a la hora de compararnos siempre me gusta mirar hacia europa que es donde están las regiones con la misma renta que tenemos nosotros y nosotras aquí me gusta mirar a los primeros de la clase a los últimos como reiteradamente parece que les gusta a ustedes pero ya que ha mencionado los lugares en los que gobernamos o participamos le diría

a lo que ocurre aquí ya se ha amortizado un treinta y dos por ciento de la deuda y sin embargo sube el gasto social un veinticuatro por ciento sin embargo aquí el endeudamiento bruto para dos mil diecisiete sube

también usted señora gorospe ha mencionado la encuesta de pobreza y desigualdades sociales publicada el veinte de marzo de este mismo año

solo ha presentado una parte no ha mencionado sin embargo que la pobreza presente deja datos negativos y se mantiene

la pobreza se situaba en el cinco coma siete por ciento en dos mil doce en el siete coma tres y en dos mil dieciséis en el siete coma uno por ciento es decir en el dos mil dieciséis con respecto a dos mil dieciocho la pobreza ha incrementado un veinticinco por ciento en euskadi y viendo que la señora castelo no viene

que en una cosa tiene razón la señora castelo y es que algo ha cambiado

el no es no del partido socialista una vez más se ha convertido en sí al partido popular

por último también sabemos que nosotros hemos hecho propuestas escuchando a la ciudadanía pero escuchando a toda la ciudadanía no solo a una parte sin embargo sigan ustedes con el raca raca que

una mentira repetida mil veces se convierte en verdad sin embargo nosotros y nosotras seguiremos trabajando por políticas y por presupuestos
que se centren sí pero que se centren en la gente eskerrik asko eskerrik asko bollain jauna

egun on berriz ere voy a intentar ir por orden señor damborenea

si nosotros hubiéramos llevado hacia adelante nuestras propuestas incluso con la que sale adelante apoyada por ustedes del nueve coma cinco por ciento más que muchos sueldos y pensiones

o la culpa es del partido popular y de su ley o no porque que me diga usted que

es del partido popular porque el partido popular aprobó una ley de pensiones que dice lo que dice y el partido popular hizo una reforma laboral que nos ha traído hasta donde nos ha traído

tenemos modelos distintos o no tenemos modelos distintos porque usted dice que sí y aquí la señora gorospe y la señora castelo que muy hábilmente no está presenta ha dicho que no

y son distintos claro que son por eso ustedes están en el acuerdo presupuestario y euskal herria bildu el acuerdo presupuestario porque tienen un modelo económico distinto al que nosotros llevamos adelante

y que esta es la dirección correcta el señor azpiazu tampoco está átese los machos señor azpiazu vienen tres años de curvas con el partido popular señora castelo eta gorospe anderea de verdad y la señora castelo me gustaría que me escuchara ya lo leerán en el diario incoherencia y postureo lo ha repetido no sé cuántas veces y coherencia y postureo el del partido socialista el del partido socialista que ha tenido que venir hoy aquí

partido socialista obrero español defendiendo aquí las enmiendas del partido popular sí señora corcuera defendiendo un acuerdo con el partido popular

y partido que ustedes han hecho que vuelva a ser gobierno incoherencia y postureo la del partido socialista obrero español sí señora corcuera que no hay alternativas claro que las hay las hemos puesto sobre la mesa

y una cosa que me ha encantado a eh bildu se le han caído muchas enmiendas por el camino no señora castelo no se le ha caído ninguna están todas

en el pacto que tenemos con los ciudadanos y ciudadanas vascas todas no como ustedes porque les tengo que recordar lo que hicieron ustedes la legislatura pasada porque la señora castelo no estaba aquí pero ustedes sí

acuerdos firmados en este parlamento acuerdos firmados por el partido socialista

para campos de fútbol rotondas y subvenciones a fundaciones de su partido señores del partido socialista

sí la gente sabe que hace mucho frío fuera pero ustedes

ya se han preocupado de buscarse una buena manta tejida de altos cargos eso es lo que ha hecho el partido socialista partido nacionalista vasco datos de la encuesta

pobreza grave se cronifica

en pobreza grave en la comunidad autónoma vasca son personas con caras con ojos

claro cuando uno solo se ahoga hasta aquí cree que es mucho mejor que cuando se ahoga hasta aquí pero se ahoga señora gorospe se ahoga igual igual se ahoga

que eh bildu se iba a vender por veintinueve millónes de euros eso es lo que creía el partido nacionalista vasco que tenía los dieciocho votos de eh bildu

mover ni un euro del acuerdo del reparto de poder entre partido nacionalista y partido socialista eso es lo que creía el partido nacionalista vasco eta horretarako eh bildu ez dago

eta esan zuen quiero un acuerdo presupuestario y lo voy a presentar el próximo miércoles

de pleno en este parlamento cuando todavía el calendario de la tramitación

pero no el señor consejero salió diciendo que iba a presentar un acuerdo aquel mismo miércoles

lo que pasó que ustedes ya tenían un acuerdo con el partido popular que ustedes ya habían firmado un ida y vuelta con el partido popular

lo de siempre que ustedes han hecho zuek ez dozuela egin a bai ahaztu zait se le está gastando ya

se le está gastando ya porque venga otra vez el comodín de gipuzkoa eta badakizu gezurretan ari zarela ez da egia

en una reunión protocolaria con el señor montoro de dos horas en madrid y usted eso lo sabe

el límite de déficit y muy hábilmente se quedó con el mismo límite de déficit que el resto de comunidades autónomas de régimen común y eso lo puede hacer el gobierno vasco el resto de administraciones públicas no tiene esa capacidad la tiene el gobierno vasco

en aquella legislatura tan aparentemente tan mala para el mundo y mucho peor para euskadi y para gipuzkoa ya ni te cuento

encima de la mesa para acordar una línea común en relación al límite de déficit e ir como pueblo

qué verdes las han segado porque para defender a euskadi ya están ellos y se valen verdad y eso es lo que nos vienen a decir y toda su justificación viene

ustedes tienen un problema para vender el acuerdo con el partido popular

ese es el problema que tiene el partido nacionalista vasco ese es el problema del partido nacionalista vasco

ese es el problema pero para eso ustedes se dedican a decir que nosotros hicimos no sé qué

no fue un consejero de eh bildu el que salió a prensa a decir creo en una reforma fiscal hay que subir los impuestos no tengo dinero para gastar

recular es más ni siquiera estuvo en el debate presupuestario porque eso sí el señor azpiazu vergüenza torera tiene no como otros no vino aquí porque ya le había dicho confebask que de eso nada monada ya le había dicho el diputado de bizkaia que de eso nada monada eta hori horrela

no en serio que me quedo en el discurso del no jamás

no señora castelo lo que no hago es venir aquí como le ha pasado a usted que me da la sensación que le hubiera gustado bastante más ser azote del gobierno que tener que ser

ese es su problema señora castelo que el partido socialista le hace los recados al partido nacionalista vasco y usted

señora pinedo ustedes han apoyado el setenta y cinco por ciento de esas enmiendas deberían tener un poquito

y en cuanto al tema de los modelos distintos es que ese es su dialéctica es la dialéctica en la que se desenvuelven el partido popular y eh bildu y a la que políticamente pretenden arrastrarnos y no nos van a arrastrar

no nuestro eso es un tema entre ustedes que para situarse dicen tenemos modelos distintos y no tenemos nada que ver con nosotros y nosotros nosotras nuestro grupo parlamentario el partido nacionalista vasco no va a entrar en esa dialéctica eso es una cosa entre ustedes y si están a gusto

pero no es el nuestro por lo tanto no nos sentimos concernidos señor bollain desde luego le reconocemos desde nuestro grupo parlamentario total absoluta legitimidad porque todo aquel

porque la sociedad vasca así lo ha decidido por lo tanto nuestro mayor respeto pero el mismo les exigimos cuando

y a lo que nosotras y nosotros representamos o no a mayoría sociales solo poner en su justa medida

no hay ninguna razón que pueda explicar que ustedes aquí en euskadi estén llevando la política y el discurso político que están llevando cuando en navarra

han modificado la ley que regula la renta de garantía de ingresos para que ya no esté indexada al salario mínimo interprofesional y se actualice

que cuestionen la capacidad para mantener la dignidad de las personas en euskadi cuando aquí la prestación la cuantía

euros para unidades convivenciales de no pensionistas y de setecientos diez euros

entre otros con su apoyo político por tanto

que con realidades tan próximas desde un punto de vista socioeconómico ustedes hagan discursos tan radicalmente distintos y eso es muy difícil que pueda calar le he puesto el ejemplo de las comunidades autónomas donde usted efectivamente en españa no porque mirara a españa

por lo tanto por eso me parecía bueno poder darle los datos de esas comunidades antes le he dado en cuanto a la progresividad de los impuestos y cómo allí donde ustedes apoyan la progresividad es menor

que en euskadi pero le puedo dar también de endeudamiento al que usted estaba haciendo otra vez referencia en aragón

tercer trimestre del dos mil quince al tercero del dos mil dieciséis es de un nueve coma siete por ciento en islas baleares de un seis coma cinco por ciento

en euskadi de un cinco por ciento en la comunidad de valencia de un siete coma tres por ciento en todas ellas mayor

sí pero apoyan y están más próximos al gobierno políticamente como mesedez

son datos de deuda según el protocolo del déficit excesivo por comunidades autónomas que ofrece el banco de españa

tren perdido tampoco esta vez eta tampoco esta vez eta kontua da zuek

mugimendu taktiko bat egiten dozue ustedes pretenden disfrazar un error estratégico a la hora de no llegar a un acuerdo presupuestario

con capacidad de gobierno y de gestión con unos movimientos tácticos que es enredar todo

de ustedes están pactando con el partido político que hace recortes que lleva la política radical

quisiera recordarles distintos acuerdos en el ámbito político que desde nuestro partido hemos desde nuestro grupo parlamentario partido en otros ámbitos hemos llegado

toda la legislatura pasada podemos decir que fuimos haciendo maniobras de aproximación y fuimos acostumbrándonos a trabajar de forma conjunta desde una perspectiva política

que sostienen y dan estabilidad a todo el ámbito institucional vasco con ustedes la legislatura pasada llegamos también a un acuerdo importante en el ámbito de la ley municipal en esta legislatura aquí hemos acordado crear y constituir la ponencia

donde ustedes si están y el partido popular ha optado por no estar por tanto son muchos

eh bildu y partido popular llegan una y mil veces a acuerdos políticos en esta cámara por tanto no es razonable que ustedes entren en esta

tampoco vamos a permitir que el partido popular pretenda inhabilitarles políticamente a ustedes como sujetos con los que se pueda llegar a acuerdos en esta cámara

política actuaremos con todo respeto pero les vuelvo a decir necesitan emanciparse políticamente emancípense

de lo que otros les dicen hoy mismo en gara podemos leer esto los valores de izquierda y la militancia el compromiso político la participación el debate siguen siendo imprescindibles ahora más que nunca porque ya no hay vanguardia en la que delegar nada

al parecer se delegaban muchas cosas en la vanguardia y ahora hay otros agentes que les siguen tutelando

arduraz erantzukizunak hartuta estos son los valores de la izquierda por lo visto a nuestro juicio los valores de la sociedad vasca

la sociedad vasca tiene absolutamente interiorizado que en el ámbito político y en todos los ámbitos es absolutamente necesario el acuerdo es un valor de la sociedad vasca

entienda que es su representante y que sus valores están identificados en ese grupo

que la cultura del acuerdo político es propia de la sociedad vasca y propia debe ser de quienes políticamente le representamos

creemos que necesitamos esperamos que la próxima vez también